este otoño se celebrará como digo en parís una conferencia en la que se sentarán las bases para garantizar el control anual mundial

porque la necesidad de una acción global ambiciosa para luchar contra el cambio climático parece cada vez más evidente aunque cierto es

creemos que no valen los cambios cosméticos que nos jugamos la transformación del mundo y muchos países han presentado ya su estrategia nacional para la conferencia de parís horregatik

aktuazioei buruz sin esperar a la documentación que enviamos que daba fe del hacer del buen hacer de los profesionales de la inspección de trabajo

eh bildu dijo en rueda de prensa que la inspección de trabajo mira para otro lado

asegurasteis que existen datos objetivos para pensar que la inspección de trabajo actúa de esta manera con esa dejadez y pasividad porque sigue criterios políticos

del consejero para que explicara lo mismo y allí se dieron

ni mira para otro lado ni atiende criterios políticos de nadie porque además de ser profesionales y esto es bueno para todos los trabajadores de euskadi

de ninguna injerencia se les falta al respeto a los profesionales de la inspección de trabajo de euskadi

por salarios de miseria jornadas abusivas y falta de normas de seguridad entre otras cuestiones la inspección dice en la respuesta que no ve nada

para intentar conciliar en relación a la denuncia y el departamento de trabajo del gobierno vasco tampoco dice nada está desaparecido en este tema aipatutako salaketan

ya les facilitó el anterior consejero hace seis meses quisiera informar de varios puntos se han atendido y cumplimentado todas todas denak

las denuncias existentes se han realizado ciento tres visitas en los tres territorios y en gipuzkoa

mensualmente el departamento aparece cuando comparece la inspección

de documentación que también se especificó y se trasladó en anteriores ocasiones no voy a detallar ahora todo el listado pero por poner algunos ejemplos se verifica

elaborado por la contratista los documentos suficientes relacionados con la seguridad y salud en el trabajo

y además la justificación de que los trabajadores reciben su salario de acuerdo con el convenio de aplicación

le hago una pregunta sincera una buena parte de los centros del país vasco que usted seleccionó como muestra para realizar de forma experimental la evaluación diagnóstica de tercero de primaria se ha negado a su celebración

de los centros públicos así como de algunas ikastolas concertadas ha tenido como consecuencia que la polémica evaluación se haya realizado solo

de este boicot de este rechazo del rechazo de una parte considerable de los centros educativos de euskadi a la prueba piloto realizada qué planes tiene su departamento para la evaluación diagnóstica que establece la lomce
y para las que teníamos nosotros nada más y muchas gracias eskerrik asko celaá andrea erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

zerikusirik la prueba piloto que hemos llevado acabo tiene el objeto de diseñar la evaluación de diagnóstico de tercero de primaria

entre seiscientos catorce y setecientos setenta y cinco respuestas en total para las competencias de euskera inglés castellano matemática y científica

resultan suficientes para sacar las necesarias conclusiones en concreto lo que se analizará es la aplicación de las pruebas en ordenador con alumnado de esta edad la duración idónea de las sesiones de evaluación y el funcionamiento de los ítems adecuado para medir lo que se pretende así como su adecuación lingüística

se elaborarán unas orientaciones criterios y modelos que serán puestos a disposición de los centros

del modo más adecuado el departamento de educación podrá completar dicha evaluación con una evaluación externa de carácter muestral sobre el sistema

constituyen una responsabilidad compartida entre el departamento y los centros el objeto es la mejora del alumnado de los centros escolares y del conjunto del sistema educativo

así que señora usted me dice que hace la evaluación en tercero y en sexto de primaria

provoque evaluaciones en tercero de primaria y en sexto de primaria ninguna en secundaria es usted consciente señora de que usted recibió una valiosa herencia

consolidación de una cultura de evaluación desde el año dos mil nueve para cuarto de primaria y segundo de primaria

de que para avanzar en la educación es preciso estabilidad en el tiempo y aunar voluntades es usted consciente de haber suscitado un problema gravísimo donde había una solución

que las evaluaciones que se estaban formulando en cuarto y segundo tan incardinadas en el sistema nunca habían

ninguna protesta ni ningún rechazo por parte de la comunidad educativa

por qué cambia usted la evaluación de cuarto a tercero donde está el informe pedagógico para hacerlo es que señora a usted no se le entiende

utilicen torticeramente sus palabras es que no se le entiende señora

no sabemos si vamos o venimos no sabemos por qué usted ha cambiado la evaluación de cuarto a tercero no sabemos por qué pone dos evaluaciones en primaria y ninguna en secundaria

a las evaluaciones diagnósticas les tienen que seguir los planes de mejora de los centros

que por cierto está abandonando el barco en medio del naufragio en alta mar si usted la sitúa

entonces quién va a hacer el plan de mejora el siguiente episodio oiga en secundaria es preciso mantener evaluaciones que teníamos nosotros usted tiene que mantener nuestras evaluaciones y utilice la creatividad porque podía haber hecho pruebas en tercero si lo hacen todos los días pero siga con las de cuarto y con las de sexto

o qué otra cosa es tener un sistema propio de enseñanza apéguese por favor a las evaluaciones diagnósticas a la cultura de evaluación
porque lo que funciona en educación no debe ser cambiado nada más y muchas gracias eskerrik asko celaá andrea

no se trata de cambiar por cambiar sino de adecuar para mejorar y sé que perfectamente que usted es una ferviente defensora de la evaluación de cuarto como no podía ser de otra forma ya que proviene de la loe de la época socialista y no son los motivos pedagógicos

la realización de evaluaciones de diagnóstico de los aprendizajes instrumentales de la competencia oral escrita y matemática tiene más sentido en tercero

así como para el desarrollo de los procedimientos lógicos y aritméticos y permite aplicar medidas correctoras de forma más temprana y preventiva

lo hemos trabajado con todos los agentes y hemos hecho una propuesta de que la educación primaria se pueda clasificar de distintas formas según la autonomía de los centros nuestra propuesta es en dos ciclos entonces es lógico que

vaya la evaluación diagnóstica y utilizaremos toda la adaptación porque se recoge todo lo anterior entonces lo que no hay que es utilizar la información de manera torticera y lo vuelvo a repetir de manera torticera en algunos intereses simplemente por equivocar

con la evaluación y por supuesto no se preocupe que tendremos la información suficiente

señoras y señores parlamentarios lehendakari miembros de señoras y señores consejeros y consejeras

iniciativa pero veo que ustedes autorizan la campaña de acoso a la guardia civil

una de sus ramificaciones ha organizado un acto de acoso contra la guardia civil en la localidad guipuzcoana de oñate lo hemos visto el próximo día haciéndolo coincidir sarcásticamente con la convocatoria democrática de la constitución de los ayuntamientos quieren

en la capital del odio es una de las reivindicaciones

y este grupo de la izquierda abertzale convocante del acto planteará

el odio del insulto de la humillación a la guardia civil esta campaña orquestada se hace intolerable conociendo como se ha desarrollado en el pasado y lo cierto es que el departamento de seguridad del gobierno vasco debería tomar cartas en el asunto prohibiendo ese atentado a la normalidad los colectivos de víctimas del terrorismo

el gobierno vasco debe dar una respuesta adecuada a lo que es un acto indigno y vejatorio

queremos saber qué medidas va a tomar el gobierno vasco para que no se celebre el acto

una veintena de convocatorias de manifestación similares para protestar contra la presencia de la guardia civil y solamente en una ocasión se ha suspendido por lo tanto ese sarcasmo al que usted alude

como usted sabe también cada vez que se programa una concentración o una manifestación que congregue a más de veinte personas el organizador o la organizadora

y en este caso una vez que se recibe la comunicación

que es conveniente hacerlo emite una resolución respetando

y ajustando los términos de la comunicación a las condiciones legales que debe cumplir y exigiendo su cumplimiento en este caso también

y sabe cómo actuar y cómo hay que aplicar la ley insisto sabe cómo hay que aplicar la ley en estos casos y es lo que va a hacer también en esta ocasión con el mismo procedimiento
que ha venido aplicando en infinidad de casos ni más ni menos señor barrio eskerrik asko beltrán de heredia andrea

pues señora consejera a mí sí me pilla de sorpresa que se permitan las campañas de insulto y de acoso

hace una semana usted y el lehendakari asistían a un acto en el que el señor urkullu lanzaba un discurso supuestamente cercano a las víctimas y el otro día covite

que tomará medidas para impedir el acto de acoso a la guardia civil que prohibiera ese acto qué pasa solo son discursos los cercanos a las víctimas y el día a día vuelven a no ser escuchadas el lehendakari no fue sincero el otro día lo de mañana es estrategia de eta señora consejera usted lo sabe usted lo sabe su campaña eso está ahí en las sentencias incluso que han relatado cuál es esa

era diametralmente opuesto convocar una manifestación rodeando viviendas familiares residen menores con el lema fuera de aquí conminándolos a marcharse y además

publicitarlo con injurias en las que se les llama txakurras no

ni por la libertad de reunión señora consejera y usted lo sabe discurso del odio humillación a las víctimas

puede haber muchas de estas cosas en un acto de esas características

en un estado democrático eso lo dicen las sentencias del tribunal europeo de los derechos humanos que usted conocerá

está sujeta a limitaciones que deben venir impuestas por los poderes públicos y usted también lo sabe y en este caso va a haber eso va a haber insultos y el interés del menor

orgánica en relación con la protección jurídica del menor la convención sobre los derecho del niño de mil novecientos ochenta y nueve

se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición

y mañana menores van a ser acosados en oñate vuelvo a decir señora consejera algunos quieren convertir mañana a oñate en la capital del absurdo y del odio

no perdona la izquierda abertzale a la guardia civil su actuación de desmantelamiento de eta señora consejera ustedes deben impedir
ese acto de acoso mañana eskerrik asko barrio jauna beltrán de heredia andrea zurea da hitza

podemos estar de acuerdo en que determinadas expresiones o eslóganes que van asociados a la convocatoria de la manifestación de mañana en oñati pueden constituir una falta de respeto absoluta hacia trabajadores públicos yo ya expresé

sentencia de la audiencia provincial de araba que decía que la expresión zipaio no constituía delito penal alguno tampoco estoy de acuerdo con que

no sea considerado como una falta de respeto a la autoridad tal y como

la audiencia provincial de bizkaia al ratificar la sentencia del juzgado de instrucción número dos de barakaldo no me consta que usted

usted está en su perfecto derecho de calificar esta iniciativa de mañana como discurso del odio y considerarla además vejatoria para las componentes de la benemérita y también para sus familias como también lo ha hecho el delegado de gobierno

comportamientos está la ley y la ley está para cumplirla y con la ley en la mano en la comunicación del acto previsto para mañana en oñati con los eslóganes de fan hemendik utzi bakean o

la manera de estimar razonadamente que concurran indicios que puedan ser constitutivos de delito y como tal potencialmente generadores de alteraciones del orden público con peligro para las personas o los bienes que es lo que dice la ley señor barrio no pida al departamento que incumpla la ley y que prohíba

que hace quince días incurrían aquellos que nos pedían que no cumpliéramos con una sentencia de la audiencia nacional con su insistencia en estos días para que la ertzaintza prohíba la convocatoria

está buscando usted lograr por la vía de la presión mediática lo que sabe que no puede conseguir por la vía judicial

sí gracias presidenta buenos días a todas y a todos señor lehendakari vuelvo a traer el asunto pinosolo el escándalo pinosolo yo pienso que en una democracia
avanzada digna de tal nombre el señor eneko arruebarrena

gerente de metro bilbao podemos observar cuál fue el dictamen de la comisión de investigación del ayuntamiento de leioa el dictamen fue contundente

concluyó este dictamen que hubo en este asunto graves irregularidades

la ley que hubo mala gestión y que hubo también derroche de dinero público este dictamen fue contundente y responsabilizó políticamente de todo ello a eneko arruebarrena dónde está hoy recolocado

está recolocado en metro bilbao a nosotros esto nos parece absolutamente lamentable e inadmisible por lo tanto tenemos que el dictamen de la comisión fue

porque lo vimos que este señor en fin se negó a comparecer en esa comisión de investigación para aclarar todo lo que quisiera aclarar no colaboró con esa comisión de investigación y además cuando compareció en el parlamento se negó a responder a las preguntas de los grupos entendemos por lo tanto que esta persona no puede seguir ocupando ese cargo y que el gobierno vasco tiene que hacer todo lo posible para

además pensamos también que en una democracia avanzada en una democracia digna de tal nombre

esto es lo que pensamos durante largos meses se ha venido negando a responder a los diferentes grupos parlamentarios sobre esta cuestión y sin embargo el partido nacionalista vasco y el gobierno vasco parece que está por encima del bien y del mal todo le resbala y nada le afecta y nosotros no estamos dispuestos a

pensamos que si imperase en euskadi la transparencia la excelencia la rendición de cuentas o la buena gestión ninguno de los dos seguiría en su puesto

se les habría destituido o se habría promovido su cese señor lehendakari qué va a hacer en relación a esto va a promover su cese va a promover su destitución

bai egun on berriro ere señor maneiro el pleno de esta cámara tomó ayer una decisión con una amplia mayoría

en la que usted mismo participó hubiera esperado de usted quien reclama siempre respeto a las decisiones democráticas de este parlamento

no voy a insistir en los argumentos que fueron profusamente expresados ayer el parlamento ha solicitado al gobierno que plantee este tema ante la comisión del código ético

esto es exactamente lo que el gobierno va a hacer y no adoptaremos ninguna decisión antes de conocer la resolución de la comisión eskerrik asko eskerrik asko oregi andrea

se niega a dar la cara en relación a esta cuestión estamos hablando de un posible caso de corrupción política muy grave y sin embargo usted se pone nuevamente de perfil señora

señor lehendakari estamos hablando de derroche de dinero público

de viajes gratuitos para cargos públicos pagados por empresas adjudicatarias estamos hablando de tráfico de influencias estamos hablando de discrecionalidad y arbitrariedad

en determinados puestos estamos hablando de representantes públicos que se niegan a colaborar con una comisión de investigación se niegan a comparecer y se niegan a responder a las preguntas de los grupos es absolutamente inamisible efectivamente ustedes han encontrado habitual compañero de viaje en este caso el grupo socialista ha echado nuevamente una mano al partido nacionalista vasco para salvarle en fin están en su derecho ellos darán las explicaciones oportunas pero pensamos que detrás de esa hay un pacto secreto firmado entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi para taparse sus vergüenzas esta es la realidad es inadmisible es inaceptable que tanto el señor eneko arruebarrena como la señora puedan seguir en su puesto después de todo lo que hemos podido conocer esto efectivamente si viviéramos en una democracia avanzada pero
vivimos en un lugar donde gobierna un movimiento nacional que es el partido nacionalista vasco eskerrik asko maneiro jauna

valora muy positivamente la gestión de la dirección de metro bilbao

esta gestión está abalada por la evolución positiva de los resultados de la sociedad una vez más le diré que se ha adelgazado su estructura directiva reduciéndose

se ha reducido el absentismo los viajeros y viajeras que utilizan el servicio del metro

cita de referencia en todo el mundo del transporte metropolitano la fiabilidad del servicio alcanza un noventa y nueve coma ochenta y seis por ciento y la puntualidad un noventa y ocho coma veintitrés

es evaluar la gestión realizada en un ayuntamiento en un ayuntamiento determinado no nos corresponde juzgarlo y además quiero recordarle algo que usted también sabe bien el señor arruebarrena no tiene ninguna causa judicial abierta en relación

egun on denoi la asociación de diplomáticos extranjeros en españa fue creada en mil novecientos noventa y ocho y agrupa a todos los diplomáticos destinados en las embajadas extranjeras presentes en españa con el fin de

en lo que llevamos de legislatura han sido ciento cuarenta los encuentros celebrados con el gobierno vasco y representantes diplomáticos de más de ochenta países

demuestra así su gran interés por conocer más y mejor al país vasco la última de estas visitas se ha producido este mismo mes de junio

en el programa de estos diplomáticos entre otras cosas se han mantenido reuniones con la

es de suponer cuando se mantienen reuniones de esta naturaleza con representantes de embajadas extranjeras en españa

unos objetivos que pueden ser comunes para con el conjunto de diplomáticos y concretos dependiendo de los países a los que representan en cualquier caso

españa en el marco de su visita a euskadi eskerrik asko ruiz andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

había sido organizada por la asociación de diplomáticos extranjeros en españa ade en colaboración con la secretaría general de acción exterior y basquetour el grupo mantuvo un encuentro de trabajo con la secretaría general en concreto con la secretaria general de acción exterior la señora marian elorza como usted bien ha apuntado también con la viceconsejera de comercio y turismo la señora itziar epalza y también con la directora de basquetour

muy completa y que el grupo conoció además de lo que puedan ser otros elementos en las reuniones de trabajo las localidades también de laguardia de gasteiz de bilbao de hondarribia de donostia de zumaia y de getaria creo que es subrayable que este encuentro permitió presentar la estrategia euskadi basque country que ya ha sido presentada en el parlamento vasco y que todos los grupos parlamentarios conocen y permitió también resaltar entre otros muchos la relevancia del proyecto donostia dos mil dieciséis como capital europea el próximo año como he dicho me pregunta usted por las valoraciones efectivamente la valoración de las reuniones de trabajo y también de la visita de la asociación de diplomáticos extranjeros para el gobierno vasco ha sido muy positiva y creo que esta misma visita junto con lo que es las relaciones que mantenemos con todo el cuerpo diplomático

de forma directa en primera persona y en profundidad la realidad de euskadi eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

es proyectar la mejor imagen de euskadi hacia el exterior en beneficio de la sociedad vasca de sus instituciones de sus empresas

definido para euskadi desde luego que diplomáticos extranjeros en embajadas españolas por su mera condición de tales suponen un grupo cualitativamente importante a la hora de

que puede generar riqueza y empleo y es lógico que se pongan todos los esfuerzos para que se vayan con una buena impresión de nuestra tierra este

deleitado existen muchas probabilidades de que vuelvan a euskadi y nos recomienden como destino y

de prescriptores de euskadi es una postura y un objetivo oportuno e importante que desde luego nuestro grupo apoyará en cualquier caso supongo que

de estos diplomáticos podría haber hecho también que dentro de su programa tuvieran

igual con los mismos objetivos para todos los representantes independientemente desu país de procedencia porque no tenemos

la apuesta económica y el foco que se hace en este sector por parte de la acción de exterior del gobierno siempre tendrá nuestro apoyo y además creo que es mucho más importante subrayar esta dimensión de internalización de empresas

de atracción de inversiones y viajeros desde luego mucho más preferible

otro tipo de acción exterior o política internacional que no compartimos como la de internacionalizar

o escenificar simulacros de estados inexistentes gracias eskerrik asko ruiz andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señora ruiz comparto con usted el criterio y además

efectivamente recuerdo que desde diciembre del año dos mil doce he y hemos atendido ciento cuarenta encuentros con representantes de ochenta países esto es más de un encuentro por semana podríamos decir y no solamente el encuentro con la asociación de diplomáticos extranjeros sino con todo el cuerpo diplomático quiero decir que destaca el interés de estas celebraciones por conocer de primera mano la realidad institucional la realidad política pero también la realidad económica y cultural de euskadi

así también como ofrecer la visión de sus países de representación y también sus intereses que son diferentes en cada uno de los casos y también para euskadi son diferentes según hablemos de américa latina según hablemos del continente americano de la unión europea o hablemos de la región de la sean o hablemos de los países de oriente medio

diferentes los intereses intereses empresariales intereses económicos intereses culturales intereses político institucionales yo creo que es

como una oportunidad el gobierno en su conjunto y yo mismo como lehendakari dedicamos tiempo el que es necesario y esfuerzo a atender a estas delegaciones que vienen a euskadi y no solamente las que vienen a euskadi

con representantes extranjeros de manera colectiva cada año organizamos también una recepción al cuerpo consular acreditado

la realidad de los países que nos visitan y también plantear oportunidades de mutuo interés en todos los ámbitos de actividad enmarco esta labor

posicionar a nuestro país en el nuevo escenario global

los objetivos las iniciativas los mercados prioritarios para potenciar la posición de euskadi en el exterior creo que la labor del gobierno acompaña un reto que se afronta en todos los ámbitos de actividad insisto no solo institucional y políticos

a finales de dos mil catorce bilbao fue incorporada

este reconocimiento internacional vino precedido por un gran esfuerzo y una apuesta decidida de instituciones sociedad y grupos políticos

fuera designada en dos mil catorce capital mundial del diseño esta aspiración no pudo ser

para hacer de la creatividad y el diseño ejes de futuro para su economía años de trabajo

se han visto refrendados por la consideración de la unesco que abren nuevas oportunidades y perspectivas de crecimiento económico para el territorio las expectativas abiertas en el sector por el impacto directo que este reconocimiento

y sus profesionales en bilbao y en bizkaia deben ser objeto sin duda

medidas y políticas por parte también del gobierno vasco y en concreto del departamento de desarrollo económico y competitividad pertenecer a la red de ciudades creativas de la unesco proporciona más prestigio más reputación y notoriedad a bilbao

abrirnos a nuevos mercados refuerza las fortalezas de las industrias creativas en definitiva estimula el desarrollo económico y social

entidades del sector de las industrias creativas tienen así una oportunidad de futuro

en plena fase de crecimiento hoy por hoy ya representa más de un seis por ciento del tejido económico en bilbao y en torno a un cinco por ciento del empleo existente situar la economía creativa como un factor clave dentro de la estrategia de desarrollo de bilbao adopta un nuevo impulso tras el reconocimiento oficial de la unesco

intelectuales más prestigiosos del mundo en competitividad económica

y embajador para el año europeo dos mil nueve de la creatividad y la innovación popularizó y divulgó en el mundo de las ideas lo que ya se ha convertido en una tendencia la industria creativa

amplio de actividades que incluye a las industrias culturales más toda producción artística cultural ya sean espectáculos o bienes producidos individualmente las industrias creativas son aquellas en las que el producto o servicio contiene un elemento artístico o creativo sustancial que incluye factores también como la arquitectura y la publicidad

como área diferenciada es ya de interés para economistas especialistas en estadística expertos en culturas de ahí viene la interpelación que le formulo a la señora consejera para que los dirigentes que elaboren políticas públicas incluido su departamento hagan de esta

un acicate a la hora de diseñar nuevas medidas todo ello refleja que cada vez existe una mayor conciencia del papel

tanto por su potencial económico como por servir de elemento vehicular para la difusión de la diversidad cultural no todos los gobiernos están convencidos de esta necesidad de que este sector sea objeto de nuevas iniciativas y acciones de promoción

con un gran consenso también social y político este convencimiento que espero y confío no pierda impulso con los nuevos gobiernos municipales y forales que se van a formar en bilbao y en bizkaia el gobierno vasco puede contribuir y mucho

y que por el contrario la oportunidad que nos brinda la unesco sea un acicate que redoble los esfuerzos del gobierno vasco para crear puestos de trabajo y actividad económica en torno al diseño y la creatividad en el territorio la propia unesco nos da razones y argumentos económicos a favor de este sector aporta un gran valor genera empleo directo e indirecto se vislumbra un gran potencial de crecimiento para los próximos años facilita la introducción de otros

contribuye a equilibrar la balanza de exportaciones contribuye al desarrollo de la confianza social permite una revalorización de marcas y productos atrae turismo facilita la movilidad genera recursos

y transforma y regenera espacios urbanos teniendo todas estas bondades y oportunidades que nos brinda este sector económico y transcurridos seis meses desde que bilbao fue incorporada a la red de ciudades creativas de la unesco señora tapia quisiera formularle la siguiente interpelación

quería saber qué propósitos tiene el gobierno vasco y su departamento

y agentes implicados en el diseño que contribuyan a crear empleo cualificado fortalecer la especialización y el tejido empresarial de bilbao y bizkaia y así contribuir

de este territorio simbolizada en su consideración de ciudad creativa por la unesco eskerrik asko

eta beraiek direla ardatz nagusiak decía que durante estas décadas hemos hecho progresos considerables en lo que es entender cuáles son las políticas principales cómo se tiene que traducir la innovación en nuestras políticas y qué tenemos que llevar adelante desde el punto de vista público para ayudar

a desarrollar productos procesos y servicios innovadores nadie discute hoy en día el papel central de la tecnología y de la innovación de la ciencia como soportes de un crecimiento y un desarrollo sostenible de un país fruto de ese convencimiento ha sido gran parte de la política industrial desarrollada en este país en euskadi durante años no ahora solamente sino durante

como motor de la economía basada desde luego en esa innovación y en ese conocimiento al encontrarse en una encrucijada entre las artes los negocios

y entre ellos de manera destacada el diseño como usted decía están en una posición estratégica estratégica para desencadenar efectos indirectos en otras industrias además no solo en ellas mismas y para usar una expresión de un reciente informe europeo para funcionar como catalizadores de innovación

este análisis debería aportar una perspectiva nueva a las formas de hacer a nuestra manera de entender la innovación la empresa y de conducirnos a tomar otro tipo de decisiones

considerando especialmente la creatividad y el diseño dentro de esos factores de competitividad es cierto que aún no está reconocida plenamente la aportación y la contribución de estas actividades de diseño de las industrias culturales y creativas

de nuestro país no lo tenemos realmente cuantificado pero se hace necesario aprovechar el potencial del que disponemos para obtener un rendimiento económico por supuesto y especialmente además considerándolo desde el punto de vista de la aportación que pueden hacer a nuestros jóvenes donde realmente este tipo de tecnologías este tipo de innovaciones son más claras que en el resto de la economía en general estos sectores pueden tener un impacto notable en la innovación además en otro tipo de industrial la innovación se ve impulsada

sino por creatividad como decíamos por diseño y por la aplicación de nuevos modelos de gestión empresariales dentro de nuestro sector económico depende en gran medida

es cierto además en ellos la calidad la diversidad de asociaciones que tenemos pueden hacer que sea determinante este tipo de agentes un ejemplo evidente

suficientemente considerado por ello realmente

estamos poniendo además un foco dentro de lo que es nuestra nueva estrategia basque industry cuatro punto cero que abarca desde realmente esos procesos iniciales de diseño

de una maquinaria de un servicio de algo que estamos poniendo en marcha pero es necesario mencionar el papel que juegan en nuevos escenarios globales

y de desarrollo territorial las ciudades y las regiones son los agentes impulsores de competitividad y crecimiento mundial en las próximas décadas eso no hay quien lo dude en estos momentos

entre sí globalmente para retener talento para atraerlo para hacer nuevas inversiones para en definitiva general desarrollo y economía en la región y para ello desde luego las estrategias de

en la transformación económica de nuestros territorios la innovación en la definición de proyectos estratégicos de país de región de ciudad desde luego es clave en la competitividad y así lo estamos observando y conscientes de ello como usted decía

han impulsado una estrategia territorial concreta y se comprueba de esa colaboración interinstitucional en el ámbito de la proyección exterior además el importante peso que tienen el diseño y la creatividad en esta estrategia desarrollada por ambas instituciones moviliza talento local y moviliza talento internacional

una colaboración intensa y además ámbitos de actuación prioritarios concretos como son el desarrollo económico la formación e investigación

de este territorio son estrategias concretas para las cuales existe una colaboración interinstitucional y para reforzar este empeño la diputación foral de bizkaia y el ayuntamiento de bilbao con el acompañamiento del gobierno vasco

en un evento que se celebró en la alhóndiga en la que participé yo además personalmente para promover todo lo anteriormente citado con una serie de actuaciones concretas además en todo ello tienen el respaldo del gobierno vasco pero no solo el respaldo sino la presencia día a día en la puesta en marcha de esa estrategia puesto que la spri la agencia del gobierno vasco participa en el board of directors de ese council

tomen posesión los nuevos responsables municipales y forales me propongo al igual que en otros territorios desde luego establecer contacto con los nuevos regidores para activar esta estrategia y desde el minuto uno compartir coordinar y realizar las actuaciones necesarias

sí gracias señora presidente señora tapia como usted ha

creativa y su desarrollo han sido objeto de planes estratégicos y políticas públicas tanto en el gobierno vasco como a nivel municipal en el ayuntamiento de bilbao y también la diputación foral de bizkaia hace mucho tiempo que se viene trabajando en esta línea pero sí es cierto

esa apuesta ha sido muy importante ha sido prioritaria

además ha conseguido aunar

sectores sociales y políticos y también ha habido mucho de empeño

las personas dan impronta también a sus políticas y eso

mi cierta preocupación por el hecho de que los cambios en los ejecutivos puedan frenar

la que bilbao ha depositado muchas expectativas el

sector es inequívoco

también y en gran medida las administraciones públicas creando condiciones y tomando políticas concretas pueden ser capaces de impulsar y favorecer esta

soy de la opinión que son principalmente las empresas y el sector afectado quienes tienen el mayor protagonismo pero las administraciones y los gobiernos deben poner las condiciones

conocer y ahondar en las políticas que se vienen realizando desde hace décadas o en los últimos tiempos

que ya conocía pero que también se agradece recordar

conocer si el hecho de que se haya considerado a bilbao dentro de la red europea de ciudades creativas de la unesco ha supuesto

o ha sido un elemento que ha hecho replantear algún tipo de medida o política desde el punto de vista

de esta apuesta de bilbao por eso ya digo que no se trata

hasta aquí porque lo conocemos sino qué vamos a hacer a partir de ahora

en estas políticas a la hora de haber obtenido este reconocimiento internacional han pasado seis meses evidentemente aunque

dos mil catorce no se tenía la constancia ni la certeza ni la seguridad de que bilbao iba a poder incorporarse a ello pues es lógico también que no estuviera contemplado

seis meses creo que también de cara a los presupuestos que se vayan a diseñar por parte de su departamento para dos mil dieciséis esta nueva condición de bilbao como ciudad creativa

hacernos dar una vuelta de tuerca más y aprovechar esta oportunidad por eso quería saber si en estos seis meses y en lo que resta

de año hay alguna medida que se haya derivado de este reconocimiento internacional por parte de la unesco

que se han continuado con las que ya había pues anuncio que

una moción en este sentido no para enmendar ninguna plana dios me libre sino simplemente para tener en cuenta este hecho que a ojos del gobierno vasco a lo mejor no tiene tanta

creo que merece por parte de su ejecutivo y su departamento alguna medida o algún impulso adicional gracias eskerrik asko

de un producto es una actividad de un alto valor dentro de las estrategias y de la forma en la que se genera nuevos productos siempre que se articule adecuadamente y en conjunto con otro tipo de factores facilitando un alto grado de diferentes en eso suele ser el objetivo

no es menos cierto que el diseño como tal no puede considerarse como un

un determinado objetivo que nos habíamos planteado previamente es decir un producto que incorpore aspectos innovadores

dentro de toda su estrategia la introducción del diseño eso es cierto le comentaba que dentro de los ámbitos de actuación que nos habíamos planteado

participamos junto con el resto de instituciones es decir está el gobierno está la diputación y está el ayuntamiento hay cuatro ejes de actuación y tienen claros cuáles son cada uno de los ámbitos de las acciones a desarrollar siendo uno de ellos la previsión del territorio bilbao bizkaia evidentemente pero

lo que es la calificación que se ha obtenido de la unesco no es un elemento adicional sino que era parte de la propia estrategia es decir dentro de esos cuatro ámbitos de actuación el último el de la proyección del territorio conllevaba como acción a desarrollar la consecución

vamos a decir un elemento adicional a lo que se venía haciendo sino parte de la propia estrategia dentro de cada uno de los ámbitos por ejemplo en el desarrollo de sectores económicos se hace especial hincapié al desarrollo de ámbitos de diseño y creatividad con diseño industrial como lo comentaba así moda mueble videojuegos audiovisual

en la promoción de estudios de grado y postgrado pues evidentemente se ha puesto especial énfasis en el diseño industrial

al ecodiseño a la formación en ecodiseño dentro de lo que era el ámbito urbano también se estaba haciendo

de la economía y de la estrategia de nuevos productos y servicios y evidentemente en lo que era la difusión internacional de acciones puestas en marcha

luego dentro de lo que es la estrategia de esos cuatro ámbitos el reconocimiento este lo que hace es poner

en el mundo sí pero además permitirnos seguir ahondando en toda la estrategia no es nada adicional sino parte de esas actuaciones que llevábamos haciendo trabajamos codo con codo con el resto de instituciones y continuaremos en la misma línea y en la misma estrategia ahondando especialmente en el ámbito internacional

desde el punto de vista de diseño e industrias culturales y creativas pero

sin actuaciones adicionales dentro de esas cuatro líneas de acción

y que seguimos trabajando insisto entre las tres instituciones y los agentes involucrados porque como usted decía las administraciones públicas solas no podemos hacerlo los agentes privados están

codo con codo también con nosotros y sobre todo son ellos los que tienen que llevar adelante la estrategia nosotros somos los acompañantes necesarios y los que trabajan para que esa internacionalización se lleve

sí gracias señora presidenta buenos días señores consejeros señora consejera el veintinueve de abril de dos mil catorce hace más de un año

en el eje cuatro de este plan y como medidas para la generación de un contexto industrial

se anunciaban entre otras medidas el despliegue de acciones de ahorrado y eficiencia

un plan de ahorro de eficiencia energética en edificios públicos y la pronta aprobación de un decreto de sostenibilidad energética por el gobierno vasco

a que en este periodo de sesiones presente dicho decreto

y nos gustaría saber en que situación está este decreto

de este gobierno y en cuanto al alcance del decreto de sostenibilidad energética que se está elaborando

en las exigencias de la normativa europea en las que la propia administración que son necesarias para que el ahorro la eficiencia energética el uso de energías renovables y el transporte sostenible dejen de ser objetivos loables y pasen a ser a convertirse en realidades constatables por ello en el decreto que se está elaborando

sino también medidas específicas y vinculadas a criterios temporales concretos que recalcan el papel ejemplarizante que debe tener una administración en este caso el gobierno vasco y resultará de aplicación en toda la administración general de la comunidad en sus organismos

así como en fundaciones y consorcios del sector público y busca precisamente ese efecto ejemplarizante en la medida en que incorpora a toda la administración vasca

esperamos tengan además su efecto en el resto de la sociedad

ha pasado ya por la oficina del control económico y en estos momentos se encuentra en la comisión jurídica asesora en la cojua

espero que sea cuestión de unas pocas semanas que podamos elevarlo a consejo de gobierno porque insisto está en el último de sus trámites y en cuanto además

que amplía lo que es este propio decreto le confirmo que se está elaborando ya el último borrador de esta ley en los plazosque se habían previsto y que en cuanto acabe esta fase de elaboración se procederá a dar curso al tramite de información pública como siempre y se prevé que el gobierno envíe al parlamento la propuesta de ley en los plazos previstos eskerrik asko

señora consejera señorías el ahorro de energía es la primera fuente de energía renovable disponible la energía más limpia la más económica la más respetuosa con el

veintisiete barra dos mil doce relativa a la eficiencia energética exige que en el periodo comprendido entre los años dos mil catorce dos mil veinte debe ser rehabilitada anualmente

de la administración o habrán de ponerse en marcha medidas alternativas para alcanzar la misma cantidad de ahorro energético señora consejera este gobierno no está cumpliendo con esta exigencia vamos lentos muy lentos

además de asumir responsabilidad asumir compromisos hay que actuar y este gobierno de momento no actúa

que es urgente intervenir actuar para conseguir un mayor respeto hacia el medio ambiente y los derechos de las nuevas generaciones y es imprescindible modificar

señorías hay que decir que el veintiocho por ciento de la población mundial consumimos el setenta y siete por ciento de la energía

es decir un setenta y dos por ciento de la población mundial sobrevive con el veintitrés por ciento de la energía restante por lo tanto señora consejera

para conseguir que en el dos mil veinte cumplamos con la directiva europea estamos en el dos mil quince

va a salir el decreto me puede decir qué grado de aplicación efectiva va a tener esto en cuanto salga el decreto qué consenso qué actuaciones tiene previstas con las demás administraciones de la comunidad autónoma vasca para que efectivamente cumplamos con los porcentajes que nos exige la directiva europea

cuatro años en los que vamos a tener que actuar muy deprisa por lo tanto entiendo que además de que nos anuncia una ley que probablemente el año que viene

es previsto un plan de medidas para aplicar ya hay administraciones que lo están haciendo por su cuenta pero desde luego creemos que queda muchísimo trabajo por hacer

nos está marcando unos porcentaje que nos exige por lo menos

por lo tanto señora consejera creo que tienen que agilizar de manera

todas las actuaciones previstas porque el tiempo se agota eskerrik asko lópez de ocariz andrea tapia andrea zurea da hitza

lo que realmente estamos haciendo se lo he comentado el decreto contempla todos los organismos de la administración general de la comunidad por tanto

no nos conformamos con eso entre tanto eso está en marcha sabe usted perfectamente que se está actuando poniendo en marcha programas de eficiencia energética en edificios directamente con el departamento de empleo y vivienda lo sabe usted

tenemos programas específicos desde el eve para que eso sea una realidad y además se han adoptado medidas y se siguen adoptando medidas de eficiencia energética en la industria y en el transporte tratando precisamente de que eso de que la eficiencia energética y

las mejores medidas que estamos implementando junto con la aplicación de energías renovables

como una energía de transición son parte de la estrategia energética no son creencias ni elementos que yo estoy comentando aquí sino reales que estamos poniendo en marcha además del decreto que insisto estará en breve puesto que la falta el último trámite y la ley que está puesta en marcha

organizaciones señaladas en la justificación hace escasos días el ocho de junio y sobre él voy a

esta interpelación en base a cuatro elementos que quiero destacar en primer lugar quiero remitirme a la reforma laboral de dos mil doce en la cual si bien no se hablaba necesariamente de ajustes

y en base a esa competitividad se planteaba una devaluación interna que es el único objetivo real que ha conseguido esta reforma laboral de tal suerte que

los salarios han perdido poder adquisitivo de forma más que evidente y por lo tanto

adquisitivo ha hecho aumentar la desigualdad salarial

es la importancia que le daba a los convenios de empresa en esto hay una curiosa coincidencia con el sindicato ela sindicato mayoritario y

lo contrario es decir su defensa de la negociación colectiva lo cierto es que su praxis deja mucho que desear a la vista de los resultados en estos momentos en euskadi hay el setenta por ciento de los trabajadores están sin renovar su convenio colectivo el tercer acuerdo por el empleo y la negociación colectiva firmado por comisiones obreras y ugt con cepyme y coe para el dos mil quince dos mil dieciséis y dos mil diecisiete

y el objetivo es iniciar la recuperación del poder adquisitivo con incrementos del uno por ciento para dos mil quince uno coma cinco para el dos mil dieciséis y

las dificultades de negociación entre estos interlocutores venía dado precisamente por una situación de deflación con lo cual había problemas para plantear incrementos estos incrementos lo que hacen es romper la tendencia de pérdida de poder adquisitivo continuado y van a contribuir

a las que me he referido porque es conocido y notorio que esta estrategia sindical que hace de la negociación colectiva la bloquea prevaliéndose de su mayor representatividad impide por tanto la posibilidad de recuperarse salarialmente poder adquisitivo perdido para muchos trabajadores

pero en este momento esto no es más que una mera contextualización para la interpelación además este gobierno también ha expresado que le gustaría poder concertar un acuerdo con el alcance logrado en madrid por el tercero acuerdo por el empleo y la negociación colectiva

si las dos centrales nacionalistas quisieran podríamos recuperar mejor esas condiciones laborales pero

y además han hecho también mención a que ese acuerdo

no merece digamos la más mínima atención cuando y tengo aquí una serie de ejemplos que no voy a citar por cuestión de tiempo cantidad de convenios de empresa

está muy por debajo de los incrementos que se pactan en este acuerdo por el empleo y la negociación colectiva el tercer elemento que quiero destacar es

porque dice por una parte que le gustaría alcanzar acuerdos como el de madrid pero realmente aparte de desearlo hace falta un empeño mayor que se visibilice un mayor empeño

más allá de la translación mimética de los acuerdos alcanzados en madrid aquí ya tenemos un espacio avanzado

y ese foro imprescindible fijó una serie de retos para este año consumida la mitad del dos mil quince vemos falta de nervio para llevar adelante

se decidió poner en marcha un programa proactivo para rehabilitación desde un criterio de edificación sostenible dirigido a trabajadores de un sector que ha acusado brutalmente la crisis como es el de la construcción nada sabemos de las líneas de actuación marcadas referidas a la formación de desempleados la incentivación en contratación ni de campañas de sensibilización para emprender proyectos de rehabilitación en comunidades de vecinos

tienen que concretar ese plan de rehabilitación pero la responsabilidad es suya la del departamento

y le corresponde a este departamento que cuenta con respaldo técnico y jurídico suficiente poner sobre esa mesa la propuesta llena de concreciones sobre las que la patronal y agentes decidan el modelo van pasando los meses y esa partida orientada a buscar salidas a quienes se quedaron sin empleo cuando pinchó la burbuja inmobiliaria no puede quedarse en el cajón lo mismo le digo con el sistema de reconocimiento de las competencias adquiridas por experiencia profesional

conocemos que se hizo un borrador de decreto que fue respaldado por los agentes sociales pero que sigue sin publicarse medio año después

ni para los desempleados de la construcción ni para los jóvenes en enero la mesa decidió un impulso de contrato de relevo para jóvenes pero los agentes sociales a la espera de un planteamiento concreto y llevan algo más de un mes a la espera desde que el departamento dijo que la remitiría coincidiendo con aquella promesa los agentes sociales el consejero hizo aquella declaración por la cual instaba a los jóvenes a no marcharse a quedarse y a aguantar pero en fin a esto hay que acompañarle como digo

cuenta de cómo va los acuerdos en la mesa de diálogo social para dar a lanbide por ejemplo un nuevo enfoque del que también teníamos conocimiento hace unos escasos días no sabiendo si eso era una noticia

de la posibilidad de remitir a diputaciones y ayuntamientos

para centrar lanbide en los que tienen alguna posibilidad de inclusión laboral pero no hay constancia de que el consejo de lanbide esté cerrando ningún plan en este sentido por tanto y más allá

y más allá de la declaración de intenciones para que ese acuerdo se pueda trasladar aquí a euskadi

por lo que le vamos a preguntar aquí tenemos líneas de actuación presupuestos cobertura política empresarial y sindical lo que nos falta es un liderazgo más apreciable más nítido más fuerte por lo tanto le preguntamos

en este momento qué piensa hacer el consejero que ya cuenta con un colchón en la mesa de diálogo social para propiciar en el país vasco un acuerdo marco sobre negociación colectiva y subidas salariales en línea con el alcanzado con el resto de españa por la patronal ceoe

a pesar de las estrategias que puedan tener los sindicatos y a pesar de la inercia que lleva el gobierno

como es público y notorio por si ello no fuera suficiente esta semana se han publicado en los medios de comunicación que

por lo tanto señor itxaso si la mayoría sindical y al menos parte de la patronal mantienen su oposición a la firma en euskadi de un acuerdo marco sobre negociación colectiva y son ellos los que deben suscribir el mismo comprenderá que la dificultad es mayúscula con independencia de la voluntad de este gobierno que bien ya sabe cuál es

debo recordar que fueron los responsables del departamento que dirijo los que a la vista de la inseguridad que surgía en la negociación colectiva por la nueva regulación de la reforma laboral en relación a la ultraactividad de los convenios colectivos se promovió y se encauzó

interprofesional que hubiera podido permitir una transición más adecuada que la que se está llevando a cabo en la aplicación de la reforma laboral acuerdo que tras un alto número de reuniones

también después de muchas reuniones con todas las organizaciones sindicales más representativas

el cuatro de diciembre de dos mil catorce con dos declaraciones no poco importantes una relativa

de las organizaciones sindicales y empresariales que defendía precisamente a ela y lab y la otra sobre el diálogo social esta mesa de diálogo tripartito se volvió a reunir el treinta de enero y en ella se alcanzaron acuerdos varios en relación con la estrategia vasca de empleo

la estrategia vasca de seguridad y salud en el trabajo y una declaración de la mesa en defensa del sistema vasco de garantía de ingresos la negociación colectiva está en estos momentos todos lo sabemos totalmente o cuasi completamente bloqueada en euskadi y la situación es muy preocupante para todos los trabajadores y para este gobierno

y trabajadoras cuyos convenios están decaídos y pendientes de recuperar

y pendientes de renovar que afortunadamente las sentencias han conseguido al menos mantener la ultraactividad en muchos de ellos

ordinaria en este año y en el año dos mil quince en euskadi solamente se han suscrito seis convenios colectivos de carácter sectorial

que cada uno mire efectivamente a donde mire en función de la responsabilidad que tiene

es consciente de esta situación y le aseguro señor itxaso que estamos manteniendo relaciones bilaterales permanentes con representantes de todas las organizaciones sindicales de todas y también de las empresariales nuestro objetivo es activar las negociaciones entre las partes con el fin de que se alcancen acuerdos

a través de la intermediación que son procesos complejos con huelgas largas en el tiempo y con una gran desconfianza entre las partes se ha intermediado en un número importante en estos y esta tarea ha tenido frutos importantes en acuerdos que a veces pasan demasiado desapercibido como en las estaciones de servicio de bizkaia cementos lemona mendiguren y zarraua feuvert las itvs de gipuzkoa etra norte

clece arkema limpiezas de getxo teleasistencia transvisa y ecn cable group entre otros fruto de ello es la demanda

las empresas y los sindicatos se hace a nuestro departamento en su condición de autoridad laboral para que intermedie en distintas situaciones tanto a nivel de asesoramiento como de intermediación algunas estrategias sindicales no son precisamente buenas para los trabajadores vascos señor itxaso claro que no

y esta interpelación de aquí se hace en parte la recibe y la responde este departamento y este consejero

debe ser hecha al conjunto de los agentes sociales y algunos de ellos más particularmente

fúnebre en relación con estos asuntos no creo que este consejero y este gobierno

yo creo que estoy de acuerdo en que tenemos que avanzar pero podemos avanzar con los que quieren avanzar y desde luego tenemos que hacer un esfuerzo para avanzar cuando se quieren avanzar y con los que no quieren avanzar dejarles en donde se quieran quedar

de diálogo social no ha avanzado más desde la última reunión no es porque este gobierno no ha hecho sus esfuerzos sino porque los agentes sociales en las comisiones correspondientes

retrasando reuniones o fundamentalmente no poniéndose de acuerdo

no se trata de poner la financiación en relación con estos asuntos sino de poner y aunar voluntades para que consigamos
mayores condiciones de diálogo de negociación y de acuerdo eskerrik asko toña jauna itxaso jauna zurea da hitza

de mis palabras está dirigida principalmente a estas centrales lo que pasa señor consejero es que este es el escenario que tenemos no es de ahora sino que ya viene de tiempo atrás denunciándose el hecho de que la negociación colectiva en euskadi

son concordantes con las que yo manejo pero sea cual sea la fuente como digo los datos son bastante elocuentes y le ponía de manifiesto el hecho de que si bien es verdad que eso es una estrategia autónoma dentro de lo que es

pero que aboca a toda una sociedad a todo un conjunto de trabajadores a una situación nosotros creemos que el gobierno

y tiene que poner el acento en denunciar este estado de cosas y le ponía como ejemplo el hecho de que la mesa de diálogo social no se convocó hasta pasada el ecuador de la legislatura porque efectivamente hay

en fin una subordinación por lo menos tácita a lo que esas estrategias están planteando y el gobierno no puede limitarse

ofrecer como única respuesta que bueno esto es así hablen ustedes con los sindicatos nosotros no podemos hacer nada más nosotros creemos los socialistas señor consejero que sí que el gobierno tiene además la obligación de decir alto y claro alto y claro las estrategias sindicales mayoritarias no van ni mucho menos en la dirección de favorecer la negociación colectiva porque es que luego además los mensajes son realmente confusos por una parte se dice que se favorece la negociación colectiva por otra parte se dijo que no que

dígase que los elementos más importantes de la reforma laboral coinciden con la estrategia de estas centrales mayoritarias en orden a orillar la negociación colectiva y a potenciar la negociación de empresa ejemplos tengo para demostrar que desde el punto de vista puramente salarial puramente salarial esos convenios de empresa que se auspician desde aquí son peores

por el empleo y la negociación colectiva plantea como incrementos salariales y ya es terrible ya es terrible no que uno pueda tener su propia estrategia sindical

neta porque estos datos en fin hablan por sí solos y realmente sobre este estado de cosas haya

o por lo menos en fin las denuncias tienen un tono menor y teniendo en cuenta la gravedad de los hechos creemos que esas denuncias tienen que tener un tono mayor

no deja de ser una aberración que puedan ir aumentando su representatividad sindical centrales que no están ni mucho menos

en favor de los intereses de los trabajadores y usted me dirá bueno pero eso dígaselo a ellos no no a los sindicatos nosotros no les vamos a decir nada porque ellos hacen el ejercicio libérrimo

pero las consecuencias son las que son y nosotros le pedimos al gobierno que

combata ese estado de cosas con declaraciones mucho más solemnes mucho más graves y con acciones que podrían pasar incluso por instar a las asociaciones patronales ya que la reforma laboral les ha dado

unilateral pues para que bueno ya que no hay posibilidad de llevar a cabo negociación de convenios colectivos en estos términos después de todo lo dicho

si la patronal exceptuando la alavesa tiene esa sensibilidad

de incorporar a las condiciones de trabajo aquello que dice suscribir al menos formal o teóricamente con los acuerdos alcanzados en madrid nada más y muchas gracias

señor itxaso tiene usted razón yo no le voy a negar

que tenemos dicho que tiene usted razón en el fondo de lo que plantea le tengo que decir

tiene este consejero que decir más claro y alto

de alguna central más que de otra está dificultando el que se puedan realizar convenios que alcancen a un amplio abanico de trabajadores bueno

tomo nota pero le aseguro que este gobierno no tiene ni temor ni temblor y menos reverencial a tratar de

habla con las cuatro centrales sindicales pero con unas más que otras y no por voluntad del gobierno porque es voluntad de los agentes sociales graduar su relación con nosotros

voy a cambiarle un poco de tercio porque no podemos pensar siempre que todo se reduce a la negociación colectiva

en un nuevo mundo que también además de las materias de intermediación y de diálogo social pues queremos ir dando forma a propuestas innovadoras para el futuro del siglo veintiuno estamos trabajando en debates y en grupos de opinión en relación también a nuevos modelos de empresa de participación de los trabajadores de promoción también de nuevas culturas organizativas

empresarios sindicalistas coinciden en la conveniencia de avanzar también hacia la superación de viejos modelos

de virtualidades sin olvidar tampoco la realidad pero modelos centrados en las personas que tengan en cuenta la dignidad los que participan en el proyecto empresarial de todos los trabajadores también de los accionistas que busque promover un empleo de calidad que busque

reparto de la riqueza en la sociedad a fin de contribuir a sociedades más democráticas no solo entre los ciudadanos sino también en los trabajadores dentro de la empresa más estables y menos conflictivas modelos avanzados que potencien y aprovechen los conocimientos competencias y capacidades de las personas implicadas incluyendo también capacidades afectivas creativas innovadoras

podemos desarrollar un modelo propio y vasco de empresa porque tenemos en cuenta en su diseño y en su funcionamiento fortalezas y debilidades de nuestra propia cultura y por tanto de las personas que en ella estamos interviniendo que tengan en cuenta las experiencias concretas existentes

dentro de sus competencias la experiencia nos indica que para promover la participación es necesario que esté apoyado por la legislación al igual que se da en otros países

nuevos modelos socio productivos que primen la sostenibilidad y no el crecimiento sostenido

el crecimiento sostenido sino fundamentalmente la sostenibilidad social

y el interés colectivo y todo ello también sin obviar que la contraposición de interés entre empresarios y trabajadores es un elemento inherente a nuestro sistema

pero que también debe ser abordada en el contexto del diálogo y de la negociación que hagan posible la superación de esa confrontación y de esa contraposición

trataremos de sumar a este debate a los distintos foros en los que se está hablando sobre relaciones laborales de la negociación colectiva y del diálogo social

en la concertación y en la mediación y además creo que lo sabe continuaremos trabajando para avanzar en los acuerdos en poder favorecer creación de empleo de calidad en liderar la intermediación haremos esfuerzos los que estén en nuestras manos no será este gobierno quien dé la espalda a ninguna solicitud de diálogo eskerrik asko

sindikatu eta patronalaren parte hartzea mugatzen du bertan la media verdad es que se ha suspendido la formación en prevención en los centros de trabajo y esta convocatoria tiene dos partes una sobre normativa que por acuerdo interprofesional de mil novecientos noventa y siete corresponde a los agentes sociales pero esta convocatoria tiene otra relativa a la formación técnica cuyo contenido lo imparten otras entidades especializadas en la materia de momento esta última no nos afecta solo la primera como luego diremos tampoco la primera

en estos momentos estamos a la espera de un informe jurídico que resuelva esta situación

desde el departamento que dirijo estamos realizando todo lo posible para que así sea en favor de los agentes sociales y para este gobierno es nuestra intención no contradecir el acuerdo interprofesional de mil novecientos noventa y siete pero la aprobación del real decreto

no es una cuestión que corresponde al gobierno vasco sino que es una normativa que nos viene dada desde madrid a la que por cierto hemos presentado enmiendas para salvaguardar todo nuestro ámbito competencial

duda barik gaian adituak diren beste erakunde batzuk burutuko dabez todas estas cuestiones se analizan y debaten en la comisión de formación de osalan tanto ela y lab que usted menciona en su justificación señora zulaika

el próximo diecisiete de junio está prevista una reunión de la comisión de formación donde se tratará el tema por lo que si estos agentes tuvieran aportaciones que realizar

y le puedo decir que personalmente y en nombre del gobierno

su forma sin formas de reaccionar a través de una durísima nota de prensa en la que dicen entre otras cosas que nuestras formas son inadmisibles

al modelo estatal que dicen que el gobierno que tanto dice defender el diálogo social se carga el acuerdo interprofesional y que dice

que puedan tener otras organizaciones y que además emplaza a este consejero

lo reconduciremos señora zulaika lo reconduciremos pero bueno será que cuidemos fondos y formas de comunicación y diálogo para que hagamos posible entre todos un entendimiento que sea más fecundo y mejor para el conjunto de los trabajadores y trabajadores y más para aquellos que pueden estar en riesgo de sufrir accidentes de trabajo eskerrik asko

egun on consejero no me negará que las aportaciones financieras

la ley de cooperativas del año mil novecientos noventa y tres modificada en el año dos mil para este fin

se considerará financiaciones subordinadas las recibidas por las cooperativas que

su vencimiento no tendrá lugar hasta la aprobación de la liquidación de la cooperativa por tanto la emisión de las aportaciones financieras subordinadas de fagor

a la aprobación de la liquidación de la cooperativa en junio de dos mil catorce el titular del juzgado de lo mercantil

aprobaba el plan de liquidación definitivo de fagor electrodomésticos y edesa el veintidós de octubre se le concedía un premio por su rápido y efectivo trabajo en la resolución del concurso de acreedores de fagor acto al que asistió el lehendakari este hecho contrasta con que a día de hoy

la amortización de las aportaciones financieras subordinadas que la ley fija y vincula con la liquidación de la propia cooperativa con que no se haya dictado ningún auto al respecto y estamos hablando de ciento ochenta y cinco millónes de euros y diez mil personas más o menos afectadas

para compensar las pérdidas habidas con las aportaciones financieras de

para llevar a cabo esta desgravación es necesario que estén amortizados los títulos y a día de hoy no lo están

hace el gobierno vasco sobre la situación en la que se encuentran las personas afectadas por las aportaciones financieras subordinadas de fagor eskerrik asko

a la liquidación de la propia cooperativa que todavía no se ha resuelto definitivamente a pesar de que esté avanzada por lo que no se puede saber el valor de estas aportaciones para que puedan entrar en funcionamiento la propuesta fiscal del órgano de coordinación tributaria en la exposición de motivos señora sarasua hace mención al cumplimiento del artículo cincuenta y siete punto cinco

una diferenciación clave en este asunto esta norma esta ley

en concreto de la composición del capital social y de su financiación pero no dice nada de la comercialización esta se produce como producto financiero

de productos financieros no de su regulación y en concreto de la suficiencia de información para conformar la voluntad de la adquirente de dichos productos y por lo tanto de la regularidad

señor consejero sigue usted sin responder a la pregunta que se hacen todos los días

subordinadas de fagor que han perdido todo su dinero que siguen pagando gastos de custodia por unos títulos cuyo valor es cero y que están suspendidos en cotización desde hace más de dos años

desde el gobierno vasco y a través de la consejería de salud y consumo y desde la dirección de kontsumobide aseveran continuamente que llevan meses trabajando en este asunto y que el órgano de coordinación tributaria impulsó desgravaciones fiscales para las personas titulares de estas aportaciones y que también han estado trabajando con las entidades bancarias para que no les cobren los gastos de custodia en definitiva aseguran ustedes que se han articulado medidas para proteger los intereses de las personas afectadas

no amortiguar el impacto del problema pero no hablan de los resultados de las medidas señor consejero porque la realidad es que ustedes no han propiciado soluciones reales

no ha sido ustedes el gobierno de las personas de unas personas que se encuentran atrapadas en una ley vasca que ha dado pie a esta situación y que deja en manos de la administración concursal de fagor su lamentable situación sí señor consejero por eso nuestro grupo parlamentario exige al gobierno que se le dé una solución digna a las personas afectadas por las aportaciones financieras de fagor isiltasuna para que al menos y dado que se han perdido todo su dinero no tengan que seguir pagando

y solo es posible a través de la amortización de los títulos ustedes asisten a la entrega de premios y reconocen la labor del administrador concursal pero debieran de asistir al drama que sufren más de diez mil personas afectadas por esta situación señor consejero

que hace falta tres años más hasta el dos mil dieciocho para dar por cerrado el concurso de acreedores de fagor para que se produzca la amortización de unos títulos que no valen nada
y para los que no queda un euro para repartir eskerrik asko sarasua anderea erantzuteko toña jauna zurea da hitza

administraciones concursales creo que más desgraciadamente y sé lo que duran duran mucho

como ya conocen todos los miembros de esta cámara se ha contado con un trabajo de investigación en materia de ley cooperativa elaborado por los institutos de derecho cooperativo de las tres universidades del país vasco para inspirar el texto articulado que se ha presentado y que se está presentando

en el pleno del consejo superior de cooperativas de euskadi el pasado mes ezagutzen duzuen zirriborro honetan

se ha introducido un recordatorio para la necesidad de que exista una obligación de entregar información suficiente clara y comprensible a los consumidores de productos de inversiones en productos financieros relativamente complejos o complejos para depende en función de la capacidad de

se recuerda que para su suscripción se deberán cumplir con las exigencias vigentes en cada momento para garantizar la existencia de dicha información suficiente clara y comprensible obligación de informar que deberán observar aquellas entidades que presten servicios de inversión a fin de cumplir con los requerimientos de transparencia y rigor informativo a consumidores que deseen adquirir dichos instrumentos financieros ayer se hizo pública una sentencia de la audiencia provincial de bizkaia en el que se anulaba

procesales por los cuales la audiencia viene a anular la sentencia de primera instancia en el fondo del asunto

para juzgarlas en su conjunto como colectivas en el juzgado mercantil sino que debe atenderse a la particularidad individual de cada demandante y por tanto

que el asunto se verá finalmente en el supremo pero comprenda

que entiendo hace lo que debe hacer legislar y proteger a los consumidores eskerrik asko eskerrik asko toña jauna gai zerrendako hamalaugarren puntua interpelazioa carmelo barrio baroja

presidenta buenos días de nuevo señora consejera

en relación con la capitalidad cultural europea dos mil dieciséis

un nuevo panorama político en san sebastián

y también recordar los compromisos y las declaraciones del parlamento vasco en relación con esta cuestión

veintisiete de febrero de dos mil catorce pues también hay que hablar

que le corresponde como administración participante en el evento parece que se despeja el panorama para san sebastián

quedan seis meses efectivamente para que donostia san sebastián desarrolle con actos y eventos culturales un programa relativo a la capitalidad cultural

han tenido las instituciones guipuzcoanas con la organización planificación del acontecimiento

este parlamento debamos de hacer un seguimiento de la situación del proyecto y por ello reclamamos información al gobierno vasco en relación con el programa cultural los actos eventos pues cómo lo ve usted o como lo

organización actualmente diseñada tenemos que recordar que

bastante ha habido preguntas ha habido interpelaciones ha habido declaraciones de este parlamento hace un año un poco más de un año

una proposición no de ley que hablaba de que el parlamento manifiesta todo su apoyo al proyecto

nos ligábamos a ese proyecto para una andadura exitosa

con la capitalidad europea de la cultura donostia san sebastián dos mil dieciséis defendiendo los foros institucionales económicos culturales oportunos ese proyecto estratégico para la ciudad el territorio y el país también se decía en esa iniciativa que

el cumplimiento de la recomendaciones del comité de seguimiento y asesoría

europea al que luego me referiré también de ceñirse al espíritu del proyecto inicial

también el parlamento vasco instaba al gobierno vasco como miembro del patronato y a tenor de las recomendaciones realizadas desde bruselas a que vele por el buen cumplimiento de las tareas encomendadas

conseguir patrocinio y apoyo económico de empresas y sectores de la iniciativa privada

ya conocido también el parlamento vasco reclamaba en ese momento que el equipo técnico de la fundación

de conformidad con las recomendaciones de la comisión europea para que se desarrolle satisfactoriamente todos sabemos que eso ha sido muy difícil con bildu por medio y

compareciera al objeto de informar sobre el desarrollo y avance de la iniciativa

esa oportunidad para que usted nos informe sobre esa situación pronunciamientos de la cámara ha habido más ha habido más ha habido más con anterioridad ratificando el carácter prioritario y estratégico del proyecto hablando de lo que tenía que ser los patronos

y bueno y tenemos que recordar lo que es importante

se puede decir de cuatro patas la diputación el ayuntamiento el gobierno vasco y el gobierno de españa en este momento tres de esas patas son

y ahí está la fuerza que usted nos tiene que transmitir hoy como consejera

más como partido o como gobierno porque yo creo que esas son las claves

la andadura decidida de aquí a dentro de seis meses ustedes tienen en su mano una parte importantísima de lo que se debe a partir de ahora en relación con ese importante proyecto de la capitalidad cultural europea todos sabemos porque ya lo hemos oído y lo hemos oído además muy recientemente

inmejorable lo ha puesto de manifiesto el ministerio el pasado

lo decía como un compromiso de verdad cierto e inexcusable hay incertidumbres en relación con

las del patrocinio privado hay incertidumbres en relación con quiénes se van a vincular desde las empresas privadas desde el patrocinio privado que además todos conocemos hay medidas para incentivarlo

es uno de los puntos débiles de la organización y desde luego

la capital cultural de europa es decir y en ese sentido eso es importante dejarlo atado desde ahora con tiempo suficiente

de marzo del comité supervisor y asesor para la capitalidad europea de la cultura

la preocupación en relación con algunas cuestiones

sobrevolaba la confección de ese informe bueno ya está ya se sabe ya sabemos cómo se va a funcionar ya no tiene que ser una preocupación pero también

cultural donostia san sebastián dos mil dieciséis el informe del comité asesor

el contenido y los temas del programa sigue pendiente de que un preocupante número elevado de proyectos aún está en fase de definición setenta y cinco por ciento frente

comité recomienda se marque como objetivo que los proyectos se adecuen y estén listos ya para ahora

un setenta y cinco por ciento era lo que estaba pendiente decía el comité que se tiene la impresión general de que

la firma de contratos bueno eso era una recomendación y hoy efectivamente nosotros queremos saber nos interesamos desde luego por esto que es importante para el país vasco no solo para san sebastián gipuzkoa para el país vasco y para españa no porque es

de españa la que va a ostentar donostia san sebastián en relación en europa con esta capitalidad cultural

de información además yo creo que en un buen marco de actuación con poco tiempo pero con claves sólidas entendemos que ahora

despejados todos los defectos posibles de gestión que hemos

con la implicación del gobierno vasco en la definitiva organización y elaboración del programa de la capitalidad cultural dos mil dieciséis para los próximos seis meses es algo importante y

zuzen zuzenean goaz europar hiriburutzara tenemos motivos para afrontar la última fase previa a la capitalidad cultural europea con optimismo y con una gran motivación como venía diciendo hemos vivido momentos complicados

a superar diferencias y situaciones de conflicto que han llevado incluso a recursos judiciales de por medio sin embargo ahora puedo decir con orgullo que el esfuerzo ha merecido la pena

y encaminarnos en la dirección correcta en ello ha influido de manera muy positiva la extraordinaria labor realizada por todo el equipo técnico que está detrás de este gran proyecto

que es al equipo técnico a quien corresponde el desarrollo y la gestión del proyecto mientras que los patronos debemos apoyar y respetar su trabajo asegurar la necesaria financiación

respeten los aspectos esenciales del proyecto aspectos esenciales como son la convivencia la creatividad social y la diversidad cultural y lingüística como factor de enriquecimiento social el gobierno vasco se ha mantenido firme en su postura y ha respetado y respetará escrupulosamente

de capitales europeas de la cultura en este sentido además este gobierno como miembro del patronato

cuanto esté en sus manos para sacar adelante junto con el resto de instituciones concernidas este proyecto cultural y social que debe servir de ayuda para unir a la sociedad

cuyo compromiso económico no ha estado del todo claro hasta la fecha y eso ha sorprendido negativamente en bruselas y así lo han hecho constar

en su reciente comparecencia parlamentaria nos lleva a confiar en que este cambio de actitud

la capital europea de la cultura dos mil dieciséis es una gran oportunidad para apostar por la cultura y el diálogo como vías para construir una mejor convivencia en la que prevalezca el entendimiento mutuo por ello

necesitamos sumar avanzar y alcanzar un amplio consenso a favor de este proyecto una implicación aún más clara y decidida por parte de las instituciones los agentes sociales y políticos y la ciudadanía en general a favor de la capitalidad europea donostia dos mil dieciséis considero

podrá propiciar un clima de entendimiento institucional que redunde en beneficio del proyecto de capitalidad cultural europea donostia san sebastián dos mil dieciséis y en beneficio de toda la ciudadanía sinceramente

que el estado está dispuesto a afrontar esta nueva etapa con seriedad institucional impulso e ilusión

en el estrado del congreso sino también en el propio patronato ciertamente

cambios que espero que en breve cuando se constituyan los ayuntamientos permitan revisar y reconducir aquellos temas

han suscitado mayor polémica y controversia estoy convencida de que este nuevo panorama institucional

y con el necesario entendimiento institucional la capitalidad cultural europea se llevará a cabo con éxito deberán quedar atrás los intentos de injerencia política deberán reforzarse la transparencia y el diálogo la ejecución de los proyectos se llevará a cabo dentro de los plazos previstos y deberá trabajarse

en atraer financiación privada la falta de apoyo privado a la financiación de la

solo puede entenderse desde la reticencia de los anteriores gestores políticos a establecer relaciones normalizadas con la empresa y con el capital privado eso debe acabar con el liderazgo real del ayuntamiento y la colaboración firme del resto de las instituciones

el otro gran reto tiene que ver con la socialización del proyecto y me consta que en este ámbito se están dando pasos muy importantes

en los que la ciudadanía había comenzado a perder ilusión la dirección ha sabido reaccionar

una gran ola de energía ciudadana aquella ola que fue precisamente la valedora de que el comité de selección de la capital europea de la cultura seleccionara este proyecto

liburuxka baten moduan edo donostia bi mila hamasein web gunean señor barrio el proyecto ha tomado rumbo adecuado

mediante la colaboración de instituciones agentes sociales económicos y políticos eskerrik asko uriarte andrea barrio jauna zurea da hitza

gracias consejera efectivamente como usted ha dicho ha habido momentos complicados

bildu al frente de la gestión de la capitalidad cultural

peor imposible eso lo hemos visto y desde luego eso es lo que hay que arreglar efectivamente usted ha hablado de optimismo yo creo que es una palabra adecuada pero parece que hay que trabajar mucho todavía

algunas preocupaciones la financiación privada en relación con captar patrocinadores o el completar eso que el informe

sin materializar no bueno yo creo que eso es efectivamente usted ha hablado del equipo

por eso es especialmente relevante que usted

por esas implicaciones en relación con lo que usted ha dicho de algunas otras cuestiones pues podemos estar de acuerdo efectivamente yo leía un titular hace poco en un periódico

palabra lamentablemente de moda en estos últimos tiempos pero bueno efectivamente esperemos que ese optimismo del que usted ha hablado

con la posición del gobierno de españa a la que usted se ha aludido tengo que hacer referencia a la última intervención del gobierno

eso es una buena clave para el trabajo conjunto con las instituciones guipuzcoanas y con el gobierno vasco porque ha mostrado el compromiso

seriamente comprometido con un proyecto que el secretario de estado dijo

profesionalidad del equipo anterior a la falta de transparencia a la falta de lealtad institucional a la falta de diálogo es decir esas eran las claves anteriores en las que se movía

requería en aquel momento al ministerio o a los patronos para hablar exclusivamente de

esas cuestiones son las que han tenido que cambiar y además ahí está respecto a la

ya se ha dicho se informó uno coma cuatro millónes en dos mil catorce uno coma cinco digo

coma cinco millónes con la posibilidad de seguir haciendo aportaciones en relación con los proyectos que se vayan presentando en ese clima de diálogo de acuerdo de negociación el interés público que se aprobó es decir buscando el patrocinio privado gracias a beneficios fiscales del noventa por ciento

hay un buen camino y también desde las instituciones centrales según nos hemos informado a través de los medios de comunicación en la comparecencia del otro día del secretario del estado de cultura en el congreso de los diputados el compromiso es un compromiso

lo que hay que coger es el timón de las instituciones

de bildu en la diputación y en el ayuntamiento y sobre todo esos manejos esas disfuncionalidades ese caos esa incapacidad de diálogo esa deslealtad institucional esa no profesionalidad de la que

se abre se abre desde luego usted lo ha dicho también el esfuerzo ha merecido la pena en relación con lo que ahora tenemos que hacer merece la pena

al acercamiento yo creo que es cumplir compromisos aportaciones presupuestarias proyectos

además eso con posibilidad de cuantías adicionales en base a los proyectos y a la seriedad de los proyectos yo creo que

fuera la política adelante la cultura yo creo que eso es lo que hay que buscar un eficaz modelo de gestión

visión europea internacional y desde luego esa es la clave y concretar usted hablaba de ilusión

también esa ilusión hay que estimularla y tiene que haber un importante esfuerzo de comunicación y desde luego para concretar ese programa cultural y vincularlo desde luego la ilusión esa de la ciudadanía

señor barrio me alegra sinceramente el apoyo decidido que hace su partido al proyecto de capitalidad europea donostia dos mil dieciséis

todas las fuerzas lo cierto es que este gobierno ha confiado en todo momento en el éxito de donostia san sebastián dos mil dieciséis y por ello

y para conseguir alcanzar la transformación social y cultural pretendida a través de las olas de energía ciudadana

bakearen itsasargia bizitzaren itsasargia eta ahotsen itsasargia tres faros que además de servir para organizar el programa en torno a tres áreas fundamentales

iluminando los valores fundamentales para una transformación social una transformación que deberá perdurar más allá del horizonte temporal de este proyecto fijado en dos mil dieciséis

social se han seleccionado cinco áreas que denominamos muelles en las que se va a intensificar dicha transformación

concebido como un laboratorio para aprovechar todo el potencial de la ciudadanía el muelle hirikia para consolidar la integración de las nuevas tecnologías

cuyo objetivo es la mediación entre los creadores y audiencias para la generación de nuevos públicos y diseño de políticas culturales más eficaces

en el contexto europeo y por último pagadi que aporta la herramienta del pensamiento crítico

para contribuir con un valor añadido a los proyectos que constituyen el programa cultural y por supuesto todo ello se realizará desde una perspectiva y visión europea

contamos con un programa cultural y social cuyas acciones están encaminadas a conseguir una sociedad más cohesionada más empática y creativa más allá del horizonte dos mil dieciséis contamos además con un buen equipo técnico y tenemos la confianza de que el nuevo panorama institucional

en cuanto al patrocinio ya se han iniciado contactos y esperemos que en breve podamos tener algo más concreto que contar

señorías la lomce se aprobó en el boletín oficial del estado

y los reales decretos de educación primaria formación profesional básica y secundaria bachillerato

salieron si no tengo mal los datos el uno y el cinco de marzo de dos mil catorce

se tenía que poner en marcha en este curso dos mil catorce dos mil quince para primero tercero y quinto de primaria pero usted el gobierno vasco

y sabe perfectamente que en el dos mil quince dos mil dieciséis en ese curso tienen que implantarse los cursos segundo

podría decirme cuándo tiene previsto publicar ese decreto en cuanto a la formación profesional básica que sustituya a los programas de cualificación profesional inicial tenía que entrar en vigor para primero en este curso ustedes no solo no han desarrollado el decreto sino que

que usted sabe perfectamente que han sido descalificados

cuándo tiene previsto usted sacar los decretos que tienen que poner en marcha esa formación profesional y con la secundaria faltan tres meses para que empiece prácticamente el nuevo curso los centros dependientes de los ayuntamientos aún no saben si van a poder impartir

y queremos saber por eso estamos esperando que ahora nos diga si usted va a comunicar cuáles son sus obligaciones si usted va a sacar los decretos en relación con secundaria y el bachillerato si van a sacar los decretos de desarrollo queremos saber cuándo le preguntaban esta misma mañana en relación con las pruebas

su si va usted a cumplir la obligación en relación con los mandamientos de la

egongo bazina esa sería su pregunta señor oyarzabal si realmente se preocupara por nuestro sistema educativo en vez de preocuparse por la implantación de una ley

este departamento para mejorar la calidad de nuestro sistema educativo un sistema educativo que todos los partidos políticos representados en este parlamento coinciden en alabar

hoy en día digno de elogio gracias al largo y fructífero recorrido realizado de manera compartida y consensuada con la comunidad educativa un sistema educativo muy superior al planteado por la lomce ya que por tanto esta nueva ley no tiene nada positivo que aportar un modelo educativo basado en el consenso y el acuerdo

por ello este gobierno continuará trabajando según lo acordado con la comunidad educativa de euskadi

lo ha hecho siempre no para implantar la lomce como usted pretende sino con el objetivo de preservar y mejorar nuestro sistema educativo
tanto sea con la lomce como sin ella eskerrik asko uriarte andrea

de todo titulares euskadi usará toda las herramientas legales para no aplicar la lomce euskadi renuncia a la insumisión para enfrentarse a la ley wert la cumplirá uriarte asume ahora

cuarta de los cuatro ejemplos que les traigo la adaptación de la lomce en euskadi necesita tiempo

una cosa y la contraria usted no sale aquí a responderme sobre los decretos porque estamos hablando de cosas concretas en relación con aplicaciones que usted tiene el deber

y en el próximo curso necesitamos saber qué piensa hacer para cumplir el desarrollo

cuándo vamos a tener los decretos que no nos lo ha dicho qué medidas piensa tomar para que las evaluaciones diagnósticas se hagan con normalidad en todos los centros educativos usted

tiene el deber de cumplir la ley luego si usted quiere disimular y que parezca que no la cumple nos parece muy bien que usted quiere darles gusto a determinados sectores y cumplir la ley

está haciendo dejación de sus funciones está además enredando la política educativa con declaraciones contradictorias y usted tiene la obligación de cumplir la ley y hacerla cumplir usted tiene que además

para que los centros educativos y en nuestra comunidad sepan exactamente lo que tienen que hacer cómo tienen que aplicar la ley y dar directrices claras también a los profesores y a las familias

si usted no ve que tengamos una línea clara me parece que no se ha puesto bien las gafas

una línea clara es lo que el gobierno junto con la comunidad educativa lleva trabajando desde hace casi dos años en la que se han establecido tres proyectos en el primero hemos obtenido el modelo educativo en el segundo hemos elaborado los currículums en el consenso y el consenso necesita tiempo necesita trabajo participación de las personas participación de todo el mundo y eso es lo que estamos llevando a cabo sí señor hombre si vamos a base de imposiciones tal y como lo hace el señor ministro wert eso no es buscar la calidad del sistema educativo nosotros estamos defendiendo la calidad de nuestro sistema educativo para eso hemos hecho un planteamiento un plan

y siempre de la mano de la comunidad educativa por favor el plan está claro otra cosa es que usted quiera meterme prisa y usted o el ministro y que dice no que tiene que estar para esta fecha porque yo lo he dicho

no hay que hacer las cosas mal porque usted lo diga las cosas se hacen bien y aquí las hacemos bien lo siento eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako